quisiera saber por qué la votación de antes no valía porque yo le he escuchado a usted

le he escuchado a usted aceptar una corrección técnica además esa corrección técnica ha sido consultada previamente con usted le he preguntado si lo hacía

para que fueran mejor las votaciones y usted ha votado ha salido un resultado y después no sé por qué
magia se ha cambiado todo quisiera que explicara la magia magiarik ez da egon erreglamendua egon da

prieto jauna perdone que insista pero si ese es el reglamento por qué usted nos somete a una votación que no es del reglamento

no tiene mayor importancia pero quería abstenerme que no que he dicho que

no hay cambio de votación ondorioz ez da onartzen

maneiro sí gracias presidenta digo que no se ha agrupado hasta ahora por lo tanto no entiendo por qué se